lehendakari consejera señorías mi grupo trae de nuevo un asunto que tiene que ver con la educación permanente de adultos interpelamos a la consejera hace dos semanas escasas para preguntarle sobre las decisiones de su departamento en relación con estos centros de enseñanza permanente de adultos aun a riesgo de repetir argumentos creo que tenemos que reiterar aquella argumentación que nos ha traído aquí a este debate hemos tenido la oportunidad además de conocer

en esta misma cámara en la comisión de educación de representantes de centros

sindicatos yo me quiero referir efectivamente al eco que se hicieron los medios de comunicación los sindicatos critican

oculta recortes el gobierno vasco pretende imponer graves recortes en la educación de adultos los directores de educación de adultos amenazan con dimitir por los recortes sindicatos y profesores contra los recortes en los centros de enseñanza para adultos según el primer borrador de la

afectaría al veintiséis por ciento de los docentes esos son recortes de prensa

anuncios y de escritos proporcionados por los representantes de los centros y de los sindicatos como decíamos el otro día los centros de educación de personas adultas epa son para muchas personas la última oportunidad

en el mercado laboral este responde a las necesidades de quienes encontrándose en una situación de desempleo buscan formarse y actualizar su formación mejorarla y obtener algún tipo de titulación que les permita obtener algún tipo

su vuelta a un puesto de trabajo en el mercado laboral también

como decíamos en su día de quienes precisan del título

certificado diploma que acredite formación básica o aquellos que quieren preparar cursos de acceso

el mandato que a través de una ley aprobada por esta cámara incorporaba la ley del aprendizaje

y comprometer a las administraciones en el impulso de la formación de las personas mayores aquellos que quieren

enriquecer su vida tratar de buscar en cualquier momento en cualquier etapa de su vida también la etapa adulta mejorar

el aprendizaje además en estos centros en los últimos años como recordábamos también en su día había acogido a muchísimas personas que llegando de otros países necesitaban aprender español personas que tienen cerradas las puertas de los institutos de idiomas inmigrantes de fuera de

necesitan y demandan aprender

de verdad en una solución para esas personas hablamos de decenas de centros treinta centros miles de alumnos que en este momento tienen una preocupación y que exigen una respuesta del gobierno vasco por eso nosotros traemos aquí una propuesta

decían repasaba antes los titulares que afectan directamente al futuro

se nos ha dicho en esta cámara que no ha habido diálogo por parte del departamento que se entregaron documentos tarde con un calendario sobrepasado en el tiempo que

lo que es más importante denuncian los sindicatos y los responsables de los centros que por detrás lo que hay es un cambio de modelo que el departamento realmente con estas decisiones lo que está tratando de plantearnos por la puerta de atrás es un cambio de modelo recortes ocultos

en realidad ese cambio de modelo que convierten a los centros de enseñanza permanente de adultos en algo mucho más reducido que prácticamente los convierten en centros de segunda oportunidad en centros en los que van a tener cabida aquellos efectivamente que buscan la titulación de la eso etcétera

pero quieren reducir absolutamente las posibilidades y las oportunidades que podían tener estos centros de cara al futuro si de verdad teníamos la voluntad existía y existe de verdad una voluntad política para reforzarlos en función también del desarrollo de esa ley de aprendizaje

como tuve la ocasión de recordarle a la consejera el otro día

en centros dirigidos prácticamente a la obtención de esa titulación

o a las pruebas de acceso a la universidad niegan la posibilidad de la educación permanente en las áreas instrumentales y básicas ya que solo

asistir a esos centros en muchos casos por eso nos preguntábamos qué pasa con las personas que necesitan adquirir o actualizar competencias que hoy se consideran básicas y que no lo eran cuando cursaron

que hoy se entienden como competencias básicas dónde queda la ley como decíamos antes dónde queda la ley del aprendizaje

octubre de dos mil trece un acuerdo mayoritario en esta cámara que pretendía entre otras cosas impulsar la tarea de estos centros

es responsabilidad de este departamento no solo no recortar sino impulsar las posibilidades que tienen estos centros a la hora de

en el desarrollo de esa ley y de esos objetivos los objetivos que recogía esa ley que aprobamos todos aquí dónde queda el impulso

ampliar esos conocimientos según recoge esa ley a nuestro juicio desde luego queda todo eso muy tocado no han explicado y desde luego no

en relación con su proyecto la aplicación de recortes sin presentar un plan esa sensación efectivamente de que no hay un análisis previo de que no ha habido

una idea clara una visión clara sobre el futuro de la educación para adultos que ni tiene sensibilidad ni voluntad para desarrollar de verdad

de los debates que se han ido sugiriendo en relación con esta cuestión hemos visto como

que nos permiten confirmar afirmar que el gobierno ha hecho números

va a afectar efectivamente a la matrícula de esos centros y que va a poner en cuestión por supuesto el futuro de muchos de esos centros recortes que posibilitarán

porque efectivamente las decisiones van a limitar el acceso a esos centros reducirán matrícula y eso permitirá al departamento seguir insistiendo en que

que le sobra hoy al gobierno del pnv hoy también podemos decir que esas decisiones limitarán las posibilidades de muchos alumnos que efectivamente se encuentran en zonas de exclusión social y laboral justo a quienes más lo necesitan a quienes más necesitan de los recursos

quiero recordar en relación con esto la supresión de los profesores terapéuticos

hay un profesor de atención terapéutica para los niños con necesidades especiales

es que aquí estamos hablando de cosas serias de cosas graves y creo que es muy importante ponerlo encima de la mesa porque yo creo que afecta efectivamente

a la línea de flotación de lo que tiene que ser un compromiso con la educación inclusiva y la educación inclusiva que es aquella que hemos venimos defendiendo en estos años lo que

nos vienen a contar es que se van a cargar justamente

aquellos profesores aquellos servicios aquellos refuerzos

prestan mayor apoyo a quienes más lo necesitan efectivamente quiero recordar que cambian los criterios de acceso los ratios procesos de los alumnos los mínimos

abrir aulas que en las aulas de castellano lo reconocía la propia responsable de uno de los centros que decía en mi propio centro en comisión de educación el otro día

estaba hablando de la enseñanza en castellano para inmigrantes

los que no son españoles aquí no había dudas en relación con esta cuestión de los de aquí y de los de fuera el castellano para inmigrantes

de álava se reducía de cincuenta y seis grupos de seis horas a veintinueve grupos de cuatro horas eso es lo que nos dijo la representante de los centros no nos lo inventamos nosotros se reduce de cincuenta y seis grupos a veintinueve grupos esto quiere decir que se va a limitar el acceso de mucha gente y se va a dejar

querían optar por estos centros se les va a dejar fuera en la calle como yo le recordaba a la consejera el otro día muchas de esas personas que no tienen ninguna opción de poder acceder a las escuelas oficiales de idiomas para las que

los centros de educación para adultos son su única oportunidad y en este momento ven como se les cierra

donde se utilizan criterios además que no serán homogéneos

que funcionarán de manera distinta en relación de unos centros con otros y de unos territorios con otros lo que va a crear agravios comparativos

la denuncia de los propios sindicatos y de los responsables de los centros que acudieron el otro día a la comisión se recorta también especialmente en las zonas rurales que se van

limitar las posibilidades de los centros en los pueblos

ellos entienden que les va a imposibilitar la generación de nuevos grupos de matrícula es decir creo que efectivamente hay elementos para que nosotros traigamos aquí primero una llamada de atención al gobierno y segundo una propuesta que sea clara nítida que compromete a esta cámara y también insta al gobierno a tomar una decisión concreta y por eso presentamos una moción que finalmente hemos decidido transar con el grupo socialista en una

de transacción una propuesta que recoge fundamentalmente el espíritu y los fundamentos de la moción que presentábamos y que pretende que esta cámara inste al gobierno vasco a la retirada inmediata

y para la elaboración de la rpt así como la resolución por la que se establecen las condiciones necesarias para la impartición de programas formativos no reglados en los centros de educación

al departamento de educación política lingüística y cultura a mantener los mismos criterios utilizados hasta ahora y esto es importante los mismos criterios utilizados hasta ahora en los centros epa

y evitar así esta situación de zozobra que viven en este momento los centros

con el curso próximo y por último instar al departamento de educación a acordar con los agentes sociales y educativos implicados la reorganización del servicio educativo de los

de la organización pedagógica resultante se configura una nueva rpt pero previo

de educación es diálogo y acuerdo sentarse en la mesa con los agentes implicados con todos

y dialogar y buscar un acuerdo y a partir de ahí a partir de esa realización de un análisis que nos parece fundamental ese análisis previo a la hora de

poder tomar decisiones y en ese momento podremos tener resoluciones que efectivamente no vengan a recortar sino que vengan a reforzar a esos centros

sailburu trataré de plantear esta cuestión

en un contexto que yo creo que es el actualmente vigente y de manera razonable cuando

cuando está al frente de la comisión internacional de la educación y establece

lo que está diciendo es que la educación a lo largo de la vida es precisamente una corriente transversal

con la cual es preciso elevar la cantidad y la calidad de educación de la ciudadanía

con o en la estrategia de lisboa del año dos mil

que eligen como orientación educativa como objetivo educativo primero precisamente el aprendizaje a lo largo de la vida porque es cierto que toda sociedad

de la competencia no solo de sus excelentes de sus relativos pocos lideres sino de toda la ciudadanía

y en consonancia precisamente tanto con el objetivo estratégico de lisboa como con el objetivo europa dos mil veinte es el de poseer como patrimonio la ley de aprendizaje a lo largo de la vida

una ley que fue la segunda de esta legislatura la primera fue una autorización de endeudamiento como bien saben sus señorías que se gestó en el gabinete

y que acertadamente este gobierno pensó debiera ser acertada por este parlamento para su debate

afirma como su objeto responder de manera eficaz a las necesidades de formación permanente y de cualificación de las personas

el desarrollo personal social profesional y la contribución al desarrollo económico de euskadi y afirma también

es la actividad realizada por las personas en ámbitos

de que concluya su formación inicial y hace especial hincapié como personas destinatarias en aquellas que están en riesgo de exclusión o marginación y en aquellas otras que tienen necesidades educativas especiales no voy a repetir los argumentos que se han dado por aquellos que me han precedido en el uso de la palabra los respaldo todos es lo cierto señora consejera que

un ordenamiento de la educación permanente de adultos la tiene que hacer la tiene que hacer no con reajustes a la baja

con la mirada en un modelo potente que responda a este contexto que estamos afirmando aquí esa orientación educativa primera que se establece como objetivo estratégico de europa dos mil veinte afirma que las sociedades

tienen que trabajar por el objetivo de que un quince por ciento al menos de su ciudadanía entre

veintitantos años a los sesenta y cinco años estén cursando formación permanente y es que usted requiere

necesita una coordinación interinstitucional para llevar a cabo precisamente esa tarea necesita usted

no solo el aprendizaje o la educación permanente de adultos sino la formación profesional necesita usted que la universidad también colabore con usted y que también instancias interinstitucionales de ámbito local

pero usted tiene que liderar ese campo usted tiene que establecer un modelo poderoso un modelo ambicioso que sea capaz de responder a este nuevo contexto porque las sociedades son cada vez más multiculturales más participativas

necesitadas de formación y cualificación para sus personas porque el empleo el desempleo preocupa mucho porque el índice de natalidad es bajo porque las personas viven muchos más años y por lo tanto hay que procurar sostener las sociedades

y para ello necesitamos mucha más cualificación en las personas

descensos de natalidad o más larga vida por eso usted tiene que ponerse en serio delante de este tema

pedir la colaboración interinstitucional que usted estime pertinente pero establecer un proyecto con un modelo ambicioso con un modelo potente que efectivamente le sirva para dar toda esa cantidad de formación y calidad de formación a las personas que están

apuntándose precisamente a esa fila y esto usted no lo cubre exclusivamente con la educación formal

no solo en ese ámbito tiene que trabajar también dando aportando lenguas aportando nuevas tecnologías

aportando precisamente ese salto psicológico que necesitan muchas personas porque tienen necesidades educativas especiales

es muy posible que usted requiera toda esa colaboración interinstitucional de la que le hablo pero eso es usted la que tiene que liderarlo es usted la que tiene que presentar un proyecto

esté ordenada que no haya despilfarro

derroche pero que ciertamente usted pueda hacer más con los recursos que tiene pueda hacer mucho más sin dejar a nadie obviamente sin este servicio porque usted tiene la obligación de cumplir el objetivo europeo que significa que el quince por ciento de personas de este país puedan tener acceso a una educación permanente de adultos si la desea nada más y muchísimas gracias

arratsalde on sailburu arratsalde on guztioi derecho al buen gobierno a modernizar las estructuras la gestión a ser transparentes

la acción de gobierno a mejorar nuestros procesos a gestionar los recursos limitados de la mejor manera posible derecho a la educación

en este debate de un tema sectorial como es el de los criterios utilizados por el departamento de educación para formular lo que será el curso dos mil catorce dos mil quince

se hacen habitualmente las mayores banderas políticas son temas claves

y es bueno que lo sean pero a menudo son utilizados con más o menos razón para el debate político llamado partidista nire interbentzioa hortik hasi nahi izan dut

ahal izan da batez ere herrialdez eta zonaldeka como decía hasta el ejercicio pasado dos mil trece dos mil catorce no se registraban las matrículas en un aplicativo del departamento y cuando en este curso al fin se ha podido hacer

es responsabilidad del departamento analizar estos datos de matriculación

efizientzia adaptatzeko ahalegina eginez seriedad rigor comunicación con los agentes implicados y flexibilidad para tratar de adaptar la eficiencia imprescindible

y centro educativo el departamento con los datos unificados pone en marcha una rpt actualizada y unificada que se presenta a los centros

se atienden varias alegaciones y se presenta otra rpt creyendo que reflejaba mucho mejor mucho más acertadamente el consenso necesario con los agentes educativos

sustanciales solicitadas por los propios grupos de interés

introducción del aprendizaje del castellano en el grado uno pero ahí yo creo que vamos más a cuestiones de criterio educativo claras

los centros de epa deben de ser educativos o asistenciales educativos un vasco

para su desarrollo aprender el idioma o idiomas de uso de aquellos países pero en ningún caso deberá ser tratado como una persona sin alfabetizar

en su día no tuvieron la ocasión de ser alfabetizadas y por ello acuden a los centros de epa para desarrollarse en materias que no pudieron hacerlo en su momento la primera la competencia en leer y escribir estamos hablando por lo tanto

educativos y técnicos por supuesto que la enseñanza del idioma oficial seguirá estando presente

esas dos situaciones que no son similares creemos que es incorrecto ganbara honetan

se habla de recortes como si estuviéramos hablando de los recortes que ejecutó

la mancha en el año dos mil doce señor oyarzabal donde cerró sin previo aviso setenta y ocho aulas de educación para adultos

las setenta y ocho aulas de adultos de la región o cuando sustituyó a los profesores interinos por becarios sin sueldo en el año dos mil trece

sin sueldo eso sí que son recortes señor oyarzabal no sigo mejor que no siga porque podríamos encontrar más ejemplos como marea verde etcétera etcétera

que pudiera haber un excedente de profesores por las bajas llamémosles así desde el segundo o tercer mes de curso pues yo creo que sí lo contemplaba usted como

hoy en día y así venía además procedimentada en las normativas de inicio de curso de los últimos

de la viceconsejera para el curso dos mil trece dos mil catorce una vez cumplido los criterios

que un número de profesores y profesoras mayor del necesario tenga que compartir diferentes turnos y o círculos o aulas que dependan del centro correspondiente

de horas lectiva completará su horario si las necesidades del servicio así lo exigen en otro centro por tanto éramos concientes en años anteriores de que

una rpt común elaborada desde el departamento para todos los centros cada centro hacía la suya de forma individual y en función de eso se solicitaban los recursos por eso era necesario sacar en este año de cara al curso que viene

para tener unos criterios para elaborar una rpt había disfunciones sí profesorado de pedagogía terapéutica había

una en álava en cambio no había ninguna en gipuzkoa por qué

no criterios generales no criterios comunes se ha eliminado el profesorado de pt sí es cierto pero se ha eliminado por principio

a los centros a no ser que un centro acuda a berritzegune o acuda

y el departamento determine que efectivamente es necesario y cuántas personas son necesarias al igual que ocurre en cualquier otro centro educativo no se está actuando de forma diferente a otros centros educativos si bien como dije también en la comisión del pasado lunes cada epa cuenta con la figura de un orientador u orientadora

las diferentes necesidades y que según convenio también tienen posibilidad de atender casos reales de necesidades especiales la gestión de los recursos por parte de la dirección del centro es muy importante y la reorganización de los propios recursos a medida que avanza el curso también lo es

a los centros nada que ver tiene la presencia real con la matriculación oficial y esto pues es entendible pero debiera de comunicarse a la dirección de centros por lo tanto esto hay que regularlo de alguna forma posteriormente a esta reorganización que se ha hecho

es así se ha conseguido ser eficientes pues llevaremos dichos recursos a otros programas estratégicos en educación con nombre y apellidos como así lo dijo la consejera y como hoy

en sare hezkuntza gelan la iniciativa compartiendo buenas prácticas y el programa hamaika esku

el actual departamento el grupo que lo sustenta somos conscientes de que había un problema de fondo este curso se han elaborado unas bases comunes para poder crear una rpt común los datos señalan que tenemos aspectos claros de mejora y de eficiencia y nos guste más o menos debemos abordar desde el convencimiento pero también desde la flexibilidad

estructura que debe de dotarse a los centros de educación para adultos creemos que es cierto que hay que dar una vuelta al modelo de la educación de adultos pues poco tiene que ver como dije el otro día las necesidades de dichos centros hace quince años a la actual realidad pero los centros de epa no están configurados como centros asistenciales sino como centros educativos enmarquemos dentro de la ley de aprendizaje a lo largo de la vida las nuevas realidades a las que pueden hacer frente y gestionar los centros de epa tal y como hemos manifestado hemos puesto

criterios comunes de funcionamiento que podrán ser adaptados con negociación pero en aras a la eficiencia eskerrik asko eskerrik asko zuri

buenas tardes el pasado quince de mayo el gobierno una resolución que pretende regular la configuración de grupos y la relación de puestos de trabajo en los centros de educación permanente de adultos lo ha hecho sin diálogo y en contra de todos o al menos nadie lo ha entendido salvo el grupo que apoya

se establecen números mínimos de alumnos para configurar grupos más restrictivos que los que había hasta ahora y se limitan los grupos de enseñanza no reglada a los recursos que existan para la enseñanza reglada en fin algunos de los portavoces que han firmado esta transaccional

el asunto y el lunes ciertamente hubo comparecencias de los sindicatos a pesar de que un servidor no estuvo presente efectivamente hemos seguido la trascripción de esas comparecencias

muy contundentes es frustrante se dijo cómo enfoca el gobierno la educación de adultos lo que no se puede hacer es recortar sin ningún tipo de plan se dijo que con los recortes se va a reducir mucho el número de clases y se quiere aumentar el número de alumnos por clase van a dejar muchos alumnos en la calle

sin evaluación y sin proyecto de futuro bajo el paraguas de la optimización de recursos se aprovecha para recortar sin tener en cuenta la función social que cumple para el próximo curso habrá setenta plazas docentes menos es decir un recorte del once por ciento de la plantilla y en muchos casos las personas

quedarán sin posibilidades de seguir estudiando

en aquella comparecencia en los cursos de epa se matriculan entre otras personas que abandonaron sus estudios se encuentran en paro y ahora quieren retomar su formación

iniciarse y profundizar en el aprendizaje del castellano informática y otras materias estos centros son una posibilidad de conseguir unos títulos o una formación para reengancharse al mercado laboral

también estudian personas mayores que simplemente quieren adquirir más cultura y optan a los cursos de materias no regladas es una función fundamental en estos momentos de crisis y un pilar como se ha dicho importante dentro de la filosofía de la ley de aprendizaje

que se aprobó hace escasos meses por lo tanto los centros de epa son muy importante para ese sector de la población que tiene más dificultades de inserción laboral en estos momentos

nos encontramos ante un nuevo recorte del gobierno vasco se trata de un nuevo recorte de un gobierno que vende que no recorta pero que mientras tanto sigue recortando una cosa es ordenar

y otra cosa es recortar recortar recorta cualquiera y últimamente recortan todos y todos critican lo que recortan otros mientras los propios nunca son tales son medidas de eficiencia de optimización o de flexibilidad lo que hacen los demás son recortes lo propio es adecuación a los nuevos tiempos mejoras de eficiencia etcétera ya digo que recortar recorta cualquiera es más difícil se necesita voluntad política y capacidad política y evidentemente todos no la tienen nosotros queremos mostrar nuestra oposición a la resolución de educación porque la educación también de las personas adultas es un derecho y con él no se puede jugar ahorros económicos que no dejan de ser mínimos si tenemos en cuenta el presupuesto del departamento pero que afectan muy negativamente

es una oportunidad para muchas personas que ven en estos cursos una salida a sus dificultades de inserción en el mercado laboral y es una oportunidad para muchas personas que buscan ampliar sus horizontes culturales sus ganas de saber etcétera por eso es intolerable inaceptable y absolutamente censurable que este gobierno se dedique a ahorrar a costa de la formación y de la educación

millónes de euros en programas inútiles o miles de euros que se dedican a publicidad y autobombo en fin por esto votaremos a favor de la transaccional estábamos de acuerdo con la iniciativa original y estamos también de acuerdo con esta transaccional

señora presidenta señora corrales

es que poner de acuerdo hoy en el sistema educativo a todos los sindicatos tiene su mérito

las direcciones de los centros educativos todos los profesores de las epas y documentos firmados por comisiones obreras por ugt por ela

qué casualidad que nadie haya comprendido

yo creo a quienes nos vinieron a contar en la comisión del parlamento vasco que es que no hay plan del gobierno que no ha habido diálogo señora corrales

que se trata de mejorar la eficiencia que esto es una cuestión de recursos de dinero al fin y al cabo gestionar los recursos

cuando ayer nos presentaban un plan de trescientos treinta y cinco millónes de euros necesidad perentoria en este momento para inyectar trescientos treinta y cinco millónes a la promoción del euskera cuando están recortando profesores aulas servicios

en la enseñanza permanente de adultos en un momento en el que miles de personas están viendo en estos centros una oportunidad para volver al mercado laboral en este momento cuáles son sus prioridades no me saque usted a cospedal y a la castilla la mancha que nos encontramos aquello en quiebra y claro han tenido que recortar de esto y de todas partes sí claro ahora

harían maravillas seguro pero con qué implicación de agentes

las han publicado con la implicación de los agentes y le he dicho con qué agentes si todos han firmado en contra si todas las direcciones de los centros están en contra si es que nos han venido a la cámara a explicar que ustedes no les han llamado

y nos han venido a decir efectivamente que ustedes que el gobierno y el departamento no tiene un plan no sabe lo que quiere hacer no se trata de ordenar es que su problema es que no tienen un plan para la educación permanente de adultos es que usted nos habla de los centros de alfabetización de adultos vamos a ver es que eso es un discurso que ya no cabe hoy

para qué aprobamos una ley el año pasado en el dos mil trece en relación con el

por qué usted tiene que volver a sacar aquí que si se les puede considerar analfabetos a los que van o no analfabetos oiga lo de los centros de adultos esto es un concepto ya superado superado en esta cámara superado

estos centros suponen una gran oportunidad si el gobierno tuviese de verdad la voluntad política de impulsarlos en todas las áreas

no solo para prestar un servicio a aquellas personas que en este momento buscando la obtención de un título

sino para efectivamente todos los planteamientos que recoge la ley mire lo más grave que de que escuchamos el otro día en la comisión más allá

todo el argumentario que yo he expuesto antes en relación con los recortes del departamento con la falta de diálogo es la denuncia que hicieron del empeño

responsables del departamento de distorsionar la imagen de esos centros ese empeño por trasladar a la opinión pública a la prensa durante estas semanas y durante estos meses de que estos centros de enseñanza de personas adultas pues que prácticamente estos es un guirigay aquí hay que meter mano que hay que ordenar porque prácticamente se dedican

a dar clases de macramé y eso es lo que nos dijeron los responsables de los centros que era desalentador para muchísimos profesionales que están allí dándolo todo y que llevan muchísimos años dedicando mucho esfuerzo

hay un departamento y un gobierno que no tienen ningún tipo de sensibilidad ningún tipo de planteamiento de futuro en relación con sus centros con su trabajo y sobre todo además que se esté trasladando esta idea de descontrol de desorganización

y nos decía termino ya señora presidenta nadie nos pregunta cuáles son los resultados de los alumnos cuántos títulos obtienen las personas que vienen aquí nadie nos pregunta sobre eso

sin analizar la situación sin hacer un planteamiento de futuro eso es lo que venimos hoy a tratar de enmendar a través de esta moción que desde luego

los centros de educación permanente de adultos trabajan

casi siempre trabajan además con población escolar difícil aportan las posibilidades para obtener el graduado escolar

imprescindible para poder seguir formación profesional bachillerato o incorporarse a un puesto de trabajo facilitan español para extranjeros imprescindible en una sociedad multicultural dan además ingles no para hacer un viaje a londres a lo mejor también pero desde luego para poder

igual que nuevas tecnologías y podríamos ampliar la lista y deberíamos ampliar la lista y yo le digo a la consejera que evite todo derroche que lo evite que si encuentra un abuso en alguna parte que lo quite

realmente no tienen razones para saber justificar su actuación

en la gestión de los anteriores y señores señoras señora corrales el pasado de este gobierno empieza a ser su propio pasado ustedes llevan casi este gobierno lleva casi dos años casi dos años y su pasado es su pasado comprenderá que a mi no me importa nada que usted

lo que nosotros hicimos pero ciertamente el gobierno lópez no tuvo este problema ustedes han de enfrentarlo

ese no era un año de nuestra responsabilidad se habrá equivocado yo se lo tolero esto

su pasado es su pasado y en consecuencia ustedes tienen que responder con sus propias actuaciones nosotros ya lo hicimos con las nuestras así que nada más y les deseo la mejor suerte y por cierto la mejor colaboración para hacer ese modelo
que necesita la educación permanente de adultos nada más y muchas gracias eskerrik asko

efectivamente señora celaá me he colado al citar recurso dos mil trece dos mil catorce pero

es exactamente igual que el curso anterior dos mil doce dos mil trece en el que usted sí estaba gestionando el departamento señor oyarzabal como no le voy a sacar los argumentos y los ejemplos de la señora cospedal alega y defiende lo que hizo la señora cospedal la supresión de setenta y ocho aulas argumentando que

contraída por el anterior gobierno por lo tanto excusas insuficientes

para su argumentación señor oyarzabal no se reducen los grupos ni en enseñanza reglada ni en no reglada no se reducen los grupos van en función de la matrícula los datos aportados en la matrícula por los propios centros son los que se toman para la elaboración de los grupos de enseñanza con la nueva resolución se habla que se cambian los criterios para la configuración de los grupos el otro día se lo dije a la propia señora

conglomerado de resoluciones de inicio de curso de años anteriores lo nuevo en este caso en esta resolución es a propuesta de las partes implicadas bajar de diecisiete a doce personas el numero mínimo

la asignación de horas a las diferentes especialidades del profesorado y los créditos

por gestión administrativa no hay nada nuevo más en la resolución del quince

que fue enviada a sindicatos y a centros de educación de adultos el diez

electrónico corroborado por la técnico itziar arrieta por lo tanto centros y sindicatos tuvieron desde el día

de mayo por lo tanto tiempo para valorar y para hacer alegaciones tuvieron sindicatos y los propios centros

con dichos centros supresión de los profesores de pt si es cierto pero creo que no se ha hecho nada diferente a lo que

y se pone en marcha en el resto de centros educativos del sistema público vasco

y por parte del departamento del berritzegune se estudie se valore y se asignen los recursos necesarios no ha habido una reducción de plantilla

que había asignados en los centros de educación para adultos y ello no quiere decir que se reduzcan las posibilidades de que muchos alumnos se queden fuera

los grupos están organizados en función de las matriculaciones vale que están metidos dichos datos en el aplicativo común que este departamento ha puesto en marcha este año y dentro de ese diez por ciento no hay

son todos los interinos que no se van a quedar en la calle también están

dicha plantilla ese diez por ciento que ha visto el departamento pues que estaba como excedente

para otros proyectos importantes también del sistema educativo público vasco

las propias matriculaciones del aplicativo y los criterios generales para todos los centros a través de las instrucciones que el propio departamento ha mandado no se destruyen

no se están limitando las posibilidades de muchos alumnos y alumnas no ha habido señora celaá reajustes únicamente a la baja ha habido a la alta también

se ha incrementado en dos la plantilla de ese centro de educación de adultos por lo tanto en algunos centros ha ido a la baja porque la matriculación así ha dicho que debía de ser y en otros centros se ha mantenido y en

como ha sido el caso este que le he puesto y que no ha sido el único por lo tanto reajustes a la baja no se ha reajustado

que es la realidad de lo que va a ser el próximo curso que el próximo curso que en septiembre se ve un repunte en la matriculación que los huecos en cada uno de los centros no son suficientes y que hay que crear nuevos grupos esas necesidades en cada uno de los grupos se valorarán por parte

se reasignarán recursos humanos si así lo fuese necesario este departamento

actual basado cómo no y como nuestra enmienda de totalidad manifiesta basado

en el desarrollo que ya se está haciendo en el desarrollo de esa ley de aprendizaje

gracias presidenta ya lamento que hoy a estas horas el tema

tengamos que discutirlo sin acuerdo de partida con lo cual vamos a tenernos que explicarnos todos lo lamento sinceramente pero bueno sobre todo porque no hay acuerdo

que hace un par de semanas interpelé a la consejera de

sobre la transferencia de los archivos históricos provinciales a las diputaciones forales transferencia de gestión que ahora está en manos del gobierno vasco por haber sido transferida a su vez desde la administración general del estado le parece al grupo socialista

no es bueno que se transfiera esta gestión a las diputaciones forales y no es bueno no porque las diputaciones forales no sean capaces de gestionar unos archivos históricos tienen un archivo que le es propio igual que los ayuntamientos en general

sino porque por un lado ha recibido la comunidad esa transferencia directamente del estado para gestionarla y es un instrumento

definir en materia de archivos que no debería de perder sobre todo por razones históricas las comunidades autónomas

políticas directamente que ahora sí tienen capacidad de regular porque no tienen una biblioteca nacional un museo nacional no tienen aquellos instrumentos en los que pueden aplicar directamente las políticas que definen entonces para una vez que nos llegan unos archivos

que son los más importantes que hay en euskadi que son para gestionar la comunidad autónoma que los hemos recibido ya no es que se haya decidido hace años en el parlamento si se quería o no transferir no no es que

y está ya en pleno ejercicio la comunidad autónoma de esa gestión de archivos históricos provinciales y ahora

la queremos transferir perdiendo la oportunidad como digo

algún elemento de política que el gobierno vasco y este parlamento tienen capacidad para decidir eso no se entiende

visión de país que es de no país la visión de país

a tener unos instrumentos comunes básicos que orienten la política en todo el territorio

si no se tienen los instrumentos para ejecutarlas la cosa ya cojea en muchas cosas tenemos los instrumentos en muchas áreas porque el gobierno vasco dispone de la inspección a ver si el cumplimiento

y de su propio desarrollo tiene lugar en unas condiciones adecuadas en las esperadas pero es que en este caso tampoco tenemos la infantería no tenemos ningún instrumento de seguimiento ni de aplicación sobre todo de política cultural en general y sobre todo en este caso

no existe nos podemos remitir a la coordinación claro y esa coordinación tiene que tener lugar en

de que pueda ser posible por eso nosotros en nuestra moción que presentamos hoy

esta sala proponemos dos cosas por un lado

en materia de gestión de los archivos históricos provinciales y por el otro a crear un órgano sectorial que incluya a todos los agentes interesados en participar

provinciales un órgano que coordine que posibilite un uso consorciado de instalaciones y de servicios o que mediante un convenio

todo el sistema nacional de archivos los archivos municipales los archivos de las diputaciones forales el archivo histórico de euskadi los archivos históricos provinciales no es que haya muchos es que cada uno tiene su característica

y su función actual perfectamente delimitada que todos ellos se puedan integrar de verdad en un sistema nacional de archivos que

el gobierno vasco no ceda un instrumento que tiene de actuación

porque los archivos no son unos lugares donde una documentación fetichista de carácter histórico al que se le da gran importancia se puede guardar

si la mayor parte del contenido de todos los archivos especialmente de los archivos históricos provinciales es una documentación

una relevancia histórica con el paso del tiempo de ahí su nombre como pueden ser el caso de los fondos de los protocolos notariales que no remiten actuaciones históricas importantes o actuaciones

muy importante para los historiadores pero tienen sobretodo la función de o pudieran tener armonizar

nacional la producción de documentos en todas las administraciones de acuerdo con unas características básicas que permitieran su uso normalizado su archivo normalizado de una forma coordinada de tal forma que se tuviera

política de archivos orientada por el gobierno vasco que sería una política cultural eficaz una que podría tener una utilidad para todos y cada uno seguiría

que le dan las leyes que tenemos y no perdería nadie ninguna de sus competencias

la realidad actual es que todo está orientado en ese sentido sin embargo la tendencia

es muy sorprendente porque resulta que reclamamos constantemente competencias del estado y en cuanto las tenemos

incluso casi si no podemos a las diputaciones forales y es que estamos hablando de una visión de país que yo creo equivocada porque

atenerse a la ley de territorios históricos que nos atenemos todos y respetamos otra cosa es sentir la foralidad desde el núcleo duro de la foralidad

puede reclamar con mayor o menor intensidad y eso parece que aquí

incluir en la foralidad cualquier cosa que se pueda coger para decir si esto puede servir porque me lo traigo al territorio histórico que lo sea

porque los archivos históricos provinciales

con el núcleo duro de la solidaridad con la tradición foral

tiene más que ver con una visión regionalista del poder por las dos enmiendas que hacen hoy el partido nacionalista vasco y el partido popular que son las dos idénticas han presentado digamos una enmienda conjunta aunque con firmas separas en papeles separados eso responde

de la derecha tradicional eso no es foralismo eso es la tendencia regionalista de apropiación del poder de las instituciones de la derecha tradicional

regionalismo sobre todo a partir del siglo diecinueve y en eso estamos no estamos

negando la foralidad no estamos negando el núcleo duro de la foralidad ni estamos hablando de la ley de territorios históricos estamos hablando de una competencia que es titularidad del estado que se transfiere su gestión porque no se puede transferir la titularidad es constitucional a la comunidad autónoma es un instrumento que es lo que más nos importa poderosísimo con visión de país de actuación

y sin que eso provoque beneficio se quiere transferir a las diputaciones forales sabiendo que provoca un perjuicio que es el desmembramiento de la actuación de esos archivos históricos provinciales y se va a hacer

semanas que se iba a hacer y eso es un desmembramiento y no va a haber coordinación porque las diputaciones forales por su tendencia tradicional

participan en los órganos de coordinación del gobierno vasco

de coordinación o de gobierno de las políticas culturales de las diputaciones forales

y no participan en ninguna y no lo van a hacer porque es su forma de actuar

como mejor sepan con los medios que tengan pero no van a coordinarse de hecho en el borrador

el gobierno no se encuentra la obligación de la coordinación entre las diputaciones forales y el gobierno se habla de qué podrán

está claro lo que ocurre aquí y es lo que está detrás de la tercera

la de los señores de bildu la señora breñas lo que está detrás es que la transferencia se va a hacer y aquí parece que cada uno cuando se sienta en un sillón

dice que tiene una visión integral de país pero como le dicen que le van a transferir una competencia dice yo la quiero

lo ha dicho la diputada foral de cultura de gipuzkoa lo ha dicho de hecho están en tratos con el gobierno

de mayo la distribución del dinero para la transferencia nada más la diputada foral de cultura de gipuzkoa ha dicho que la quiere

sin embargo la enmienda de la señora breñas del grupo parlamentario eh bildu hace una larga cambiada

a los territorios históricos y habla de hacer con la participación de los agentes del sector definir las funciones de cada administración tanto a nivel

en fin bien pero cómo que definir las funciones pero es que van a cambiar todas las leyes

constitución estatuto de autonomía ley de territorios históricos

van a reunirlos para hacer una modificación legislativa de una especie de ley

en euskadi un poco de en fin luego habla también de que partiendo de esas conclusiones las que saquen las diputaciones los ayuntamientos y tal se haga una ley de ordenación de dichas competencias oiga que la ley se está haciendo

en el mundo feliz hablando de que vamos a hacer esto cuando

a ver como se vuelve marcha atrás y cuando el gobierno está elaborando un proyecto de ley

miren estamos en la diputación igual ahora mismo no nos sentimos foralistas del todo pero aquí le amarga un dulce y me quedo con la competencia

cuando escribe lo que escribe en su enmienda por lo tanto

ya que voy a perder la iniciativa que tiene mucho sentido que el grupo socialista que hoy está defendiendo una visión integral de país y que

y otros con disimulo defienden una visión regionalista ni siquiera foralista del poder muchas gracias eskerrik asko reyes jauna

buenas tardes presidenta señorías lehendakari consejera señor reyes no nos ha convencido

bonito es un debate en el que nosotros nos encontramos cómodos porque tenemos

ya sabía el señor reyes cuando presentó esta moción cuál iba a ser la postura

la de la foralidad que en este tema también como en la mayoría la foralidad es sinónimo de buena gestión

de desarrollo positivo también señor reyes en materia de archivos creo señor reyes y con todo el cariño que esta iniciativa es fruto de la

que tienen ustedes por no entender que nuestro entramado

que nuestro entramado competencial es un valor a desarrollar a seguir desarrollando no es un valor a sustituir a finiquitar y eso nosotros lo tenemos muy claro precisamente esa es la visión de país de este país

su moción señor reyes el parlamento vasco insta al gobierno vasco a seguir ejerciendo las funciones y servicios en materia de gestión de archivos de

a no ceder esa competencia a las diputaciones forales pues eso no está bien además no es útil señor reyes y en relación con crear un organismo sectorial pues no es necesario esa coordinación ya existe ya existe ya se sabe en este país mucho de coordinación de colaboración institucional entre las administraciones forales y la administración central

nosotros consideramos que aprobar esta moción sería un retroceso y que no sirve para nada impedir que los órganos forales

en ese sentido no estaría nada bien impedir esa especialización y ese desarrollo y ampliación de esa especialización y de ese trabajo que saben hacer y eso como le decía antes ya sabía señor reyes cuando presentó esta iniciativa cuál iba a ser la posición

últimamente ya es más normal que el partido socialista nos pida en esta cámara que se limite algo que funciona bien vuelvo a decir en relación con este planteamiento político institucional para nosotros la ley de territorios históricos en su título primero de las competencias de las instituciones de la comunidad autónoma y de los órganos forales ese capítulo dos

los órganos forales de los territorios históricos tienen competencia exclusiva que ejercerán de acuerdo con el régimen jurídico privativo de cada uno de ellos en las siguientes materias pues ahí está archivos el punto número doce tienen experiencia ya lo conocen hace mucho tiempo por ello

la transferencia de la gestión de los archivos de titularidad del estado a la comunidad autónoma vasca pues debe y deberá

con los acuerdos necesarios trasladarse a los territorios históricos

en relación con esos archivos de titularidad del estado nosotros lo entendemos con toda la normalidad

es una actitud lógica la que tiene que abordar el gobierno vasco y la que de alguna manera ya expresó el otro día

lo que dijo el otro día la consejera hay en los archivos y en la gestión de los archivos forales

de los órganos de los territorios históricos a través de sus archivos forales

una gran trayectoria en todo lo que tiene que ver con la documentación histórica con la digitalización

con la administración de sus archivos con la documentación la preservación eso es así eso lo conocemos y además seguramente que usted también lo hará lo conocerá seguramente en bizkaia eso sí

algo que queda pendiente y eso sí que también nosotros tenemos que estar vigilantes hay que fijar las condiciones de esa transferencia

para que estén bien para que las diputaciones y el gobierno vasco se entiendan y efectivamente eso sea lógico hacer que las cosas que han funcionado bien lo sigan haciendo con esta ampliación fruto de la transferencia del estado es lo que nosotros

van a poder funcionar así además ampliando sus responsabilidades están preparados para ello

durante mucho tiempo afortunadamente y entendemos que así nosotros no compartimos señor reyes

la reciente afición del socialismo vasco partido socialista de euskadi a ese neocentralismo vasco nosotros no lo compartimos se han convertido ustedes teóricamente en este momento

desde hace unos pocos tiempos en militantes en el neocentralismo vasco pues nosotros no estamos ahí ustedes descalifican el foralismo lo ha hecho usted en su intervención pero lo descalifican

fundamento con voluntarismo y hay que ir un poco más allá porque es un modelo señor reyes que funciona muy bien y que está anclado

nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad es un debate que ya mantuvimos en esta cámara

y décimos que el parlamento vasco considera que la gestión de archivos de titularidad estatal transferidos a la comunidad autónoma del país vasco debe ser competencia de las diputaciones forales

los procedimientos legales administrativos para su materialización garantizando la financiación para su desempeño y ahí está la coordinación ahí está

otros órdenes normativos la futura ley las normas existentes actualmente

señor reyes normalidad legal buena gestión y negociación entre las instituciones muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

está cumpliendo una previsión contenida en el acuerdo de la comisión mixta de transferencias además la está cumpliendo siguiendo la voluntad manifestada

y en cuanto a lo que hoy más directamente nos atañe lo hace cumpliendo el acuerdo del pleno de este parlamento que aprobó el día treinta de mayo de dos mil doce una moción con el siguiente mandato el parlamento vasco considera que la gestión de archivos

recientemente transferidos a la comunidad autónoma del país vasco debe ser competencia de las diputaciones forales por lo que insta al gobierno y a las tres diputaciones a poner en marcha

garantizando la financiación para su desempeño este texto que también hoy presentamos como enmienda de totalidad a la moción de su grupo no

de la cámara hoy sin embargo el partido socialista decidió de manera unilateral no cumplir este mandato hoy haciendo gala de una prepotencia increíble o algo peor el grupo socialista en el que participan varios miembros de dicho gobierno

puesto que el anterior gobierno no cumplió el mandato de este parlamento porque iba en contra de sus intereses político partidistas hoy censuramosal gobierno actual por haber comenzado a cumplir dicho mandato y pedimos a esta misma cámara que exija al gobierno

realmente extraordinario digno de pasar a los anales del parlamentarismo lo cierto es que la propuesta se califica sola señor reyes en esta primera intervención y como no quiero que se me vaya por las ramas solo le voy

en base a qué criterio democrático defiende que el gobierno incumpla el mandato indubitado del parlamento por qué considera que el actual gobierno debiera cumplir su propuesta si la misma se aprobara cuando ustedes mismos despreciaron el mandato de esta cámara sobre la misma cuestión acaso

al supremo saber del partido socialista porque esto es lo que nos piden hoy aquí ya que nadie había traído siquiera a debate el incumplimiento del anterior gobierno piden que el parlamento avale el incumplimiento de su propio mandato y que censure al actual gobierno por cumplirlo es decir

y luego le censuro por hacerlo cómo califica esto
espero que conteste a las preguntas que le he realizado eskerrik asko arieta araunabeña jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza sí gracias únicamente para decir a un servidor señor reyes le ha convencido

en fin votaremos a favor de su iniciativa original mantenemos los mismos principios que defendimos en el año dos mil doce y con el voto favorable de upyd espero que al señor reyes su derrota en la votación se le haga

siempre pone no el dedo en la llaga sino la sal y siempre en vez de buscar soluciones o tratar de encontrar caminos que podamos transitar usted pone chinchetas a ver si el que actúa en política

el acuerdo de la comisión mixta está recogido en un documento oficial publicado en el boletín oficial del país vasco y del

legislatura lo tengo aquí si quiere se lo leo y no dice

a las diputaciones forales la competencia de gestión de los archivos provinciales históricos me ha emocionado porque eso reclamar que se cumplan los mandatos de este parlamento fíjese se lo compro y voy a hacer una relación de todos los incumplimientos que simplemente la consejera de agricultura que la tengo delante ha hecho respecto a iniciativas mías

y de todas las demás que se han aprobado en esta legislatura y que no ha hecho ni puñetero caso este gobierno menos dignidad estando donde estamos afectada y más realismo yo entiendo perfectamente que usted diga yo quiero que se vaya a las diputaciones forales yo le argumentaré diciendo por qué no pero no diga esas cosas de incumplimiento de proposiciones de ley

cuando está incumpliéndolas todos los días que es verdad y le puedo poner ejemplos

industrias culturales simplemente por ejemplo ya le voy a traer más que tenemos una cosa mañana pendiente es verdad

argumente políticamente y déjese de enfatizar cuando no tiene razones

no las respeta porque esto es una decisión de un gobierno que usted puede querer que se cambie y el gobierno actual efectivamente puede cambiarlo yo puedo discutir políticamente

quién se ha creído que es para tratar así a un lehendakari quién se ha creído no lo he hecho yo nunca con el actual no nunca

está bien continuamos partido popular vamos a ver han presentado ustedes la misma iniciativa

perfecto usted ha autorizado señor barrio ya digo porque defienden lo mismo es decir desde un punto de vista de derecha racionalista

una cosa es la foralidad otra cosa es el núcleo de la foralidad

la actitud política el interés político de una derecha regionalista que eso también forma parte de su tradición igual que el partido nacionalista vasco eso es así es verdad entonces esto no es un ataque a la foralidad ni mucho menos los socialistas no cuestionamos las competencias de los territorios nadie está hablando aquí

que están desmembrando una competencia y la están haciendo más ineficaz

ese es el asunto porque usted señor barrio dice que es más eficaz

que lo gestione una diputación foral es decir que la gestión del gobierno vasco es mala

y que usted cree que haya una competencia de un gobierno vasco que la tiene y que la puede ejercer sin demérito sin quitar ninguna competencia a los territorios históricos que tienen sus archivos y que van a seguir

utilice algún argumento que tenga algo más de peso no es verdad que ya existan coordinaciones

no es verdad en materia de cultura todos los órganos que hay son consultivos las diputaciones forales pueden

de hacer nada de lo que allí se puede dirimir y el gobierno no controla nada de lo que hacemos no puede

de una política cultural común no hay nada que obligue no es verdad si se tiene una competencia que puede ordenar eso

por qué la va a ceder el gobierno vasco por qué dónde está la ventaja

porque precisamente es el gobierno vasco el que tiene más capacidad para transmitir el conocimiento que hay en esos archivos son los archivos de más contenido y calidad

de ese tipo tiene que soltarla y fíjense ustedes dicen ustedes que en fin esto es una cosa de socialistas

es mentira en el dos mil hay un decreto firmado por una consejera nacionalista la señora

en el que dice en el artículo veinticinco referente al sistema nacional de archivos de euskadi que corresponde al órgano gestor del sistema nacional de archivos

gestionar los archivos de titularidad estatal en el marco de los convenios que suscriban con la administración del estado no solo querían la competencia quería gestionarlo por una política de gobierno el gobierno vasco

la da a las diputaciones para desmembrarlo y no para que sea algo
más eficaz reyes jauna amaitzen joan sí señora presidenta termino

en fin está bien con palillos construir un discurso pero hay un archivo histórico de euskadi hay archivos históricos pronunciales

de las diputaciones forales están los archivos municipales cada uno tiene contenidos distintos funciones diferentes cada uno de ellos no solapa con los demás tienen contenidos distintos

al archivo histórico de euskadi y de lo que se trata es de un órgano que permita coordinar eso
no de quitar competencias a nadie pero tampoco al gobierno vasco eskerrik asko reyes jauna

gracias señora presidenta brevemente pues sí sí es

hombre no es un obús en su línea de flotación pero sí sí es un ataque y sobre todo este debate a través de una proposición no de ley

tiene que haber otra fórmula que impulsen procedimientos legales

trata de plantear pero no en este caso a través de una proposición

sin potencia normativa y es que además es normal lo que usted decía las competencias que se negocian entre la administración del estado y la comunidad autónoma dentro del seno de la comunidad autónoma pues cómo se vaya desarrollando en función de su entramado legal y de sus leyes y de su distribución competencial eso tiene que ser así eso usted lo sabe también y luego

el real decreto el real decreto es que lo que al final consagra

es lo que yo le digo es la distribución interna en el país ese real decreto además lo firmaba

con el gobierno zapatero y decía en el anexo decía que la administración general del estado y la comunidad autónoma vasca

ya se refería a eso o sea ya reconocían esa situación

en ese sentido yo creo que estamos actuando bien quienes defendemos

la posición que usted descalifica no sé sano regionalismo o algo así ha dicho

sí que están bastante más desenfocados en esa posición negacionista de la foralidad en esa posición del neocentralismo vasco que no es bueno es decir que nadie nos ha sabido explicar desde esas filas suyas ha habido algunas coincidencias parlamentarias con el señor maneiro

pero nadie todavía nos ha sabido explicar ese negacionismo vasco y esa andadura hacia el neocentralismo vasco señor reyes

la normalidad es decir lo que pedimos nosotros es la normalidad basado en que los archivos forales

funcionan bien tienen experiencia tienen profesionales tienen especialización materiales tienen instalaciones y funcionan bien lo han hecho bien y lo reconoce todo el mundo y son de referencia y algunos renovados recientemente

el de vitoria es el más grande el que tiene más medios veinte kilómetros de archivo cinco mil metros cuadrados en el archivo de vitoria cabe la mitad del archivo

de españa cabe dos veces el archivo de indias es decir está preparado y además profesionales de primera instalaciones de primera

de un modo extraño usted ha utilizado en su intervención frases como apropiación del poder de la derecha tradicional nos sentimos propietarios del sillón

etcétera me pregunta a ver quién soy yo para tratar así al lehendakari pues mire esta mañana una compañera suya

soy un parlamentario un mero parlamentario que en el desarrollo de su función lo que está constatando es que el lehendakari hoy va a votar que se pida a esta cámara que avale su incumplimiento de un mandato de la misma

ese es el trato que yo le he dedicado al lehendakari como miembro del gobierno y que hoy va a votar eso exclusivamente si eso es para usted ofensivo usted verá

hacia mí para intentar llegar a ningún acuerdo en este tema sea claro bueno la verdad es que a nadie se le escapa que en casos concretos y por motivos objetivos

pero no es el caso que nos ocupa porque el partido socialista censura el gobierno actual

que cumpla el mandato que ellos no quisieron cumplir el debate ni siquiera se había planteado en el cumplimiento o incumplimiento del gobierno sino la desfachatez que usted ha tenido para traer aquí

mire usted la conclusión que se puede sacar después de escucharle a usted es que los mandatos parlamentarios

para el gobierno si coincide con sus planteamientos político partidistas

esa es la única conclusión que se puede sacar de su intervención señor reyes utilizar como justificación para su cacicada una visión de país contrapuesta a la nuestra

tan concreta como la que nos ocupa es de una simpleza alarmante y de un déficit democrático muy preocupante entiendo

como es usted tenga lógicas dificultades para distinguir entre modelos de organización simple o compuesto o unitario y complejo

entiendo también que le moleste una forma de organización que choca con su concepto imperialista del estado pero aunque usted haya introducido esta cuestión

y sin ningún rigor es un debate que evidentemente no procede en este trámite por las evidentes restricciones tanto de tiempo

del debate de hoy en cualquier caso y por respeto también a los demás grupos voy a hacer algunas consideraciones sobre el modelo organizativo de los archivos creo que al abordar la cuestión hay que reparar en cuáles son los fondos documentales qué información generan y qué tipo de gestión se debe realizar

y cómo acceder a ellos una gestión única y centralizada ni siquiera supone como bien saben que todos los fondos deban estar en el mismo sitio y tampoco se contradice en absoluto

usted señor reyes contraponiendo una supuesta visión nacional contra una foralista o confederal este planteamiento de visión nacional de los socialistas no es creíble

por si alguien pica lo de visión nacional que dice

y para que quede claro leo literalmente lo que decía la portavoz socialista aunque usted ha utilizado hoy el término óptica de país o algo así o punto de vista de país

decía naturalmente que luego los archivos pueden funcionar en red menos mal pero no me negarán que seríamos una nación

sin tener un archivo histórico propio como están teniendo en otros lugares y desde luego cataluña es un buen ejemplo hombre señor reyes desde cuándo defiende el grupo socialista

es lo que nos quieren decir pero a quién quieren engañar tan simple nos considera

decía la señora consejera cristina uriarte con motivo de la interpelación de la que trae causa

que el gobierno está trabajando en la elaboración del anteproyecto de ley de los documentos y archivos del país vasco mediante lo cual se sentarán las bases para la configuración

de documentos analógicos y electrónicos y de archivos también se procederá a regular el sistema de archivos de euskadi así como sus integrantes y los órganos de gestión asimismo se regulará la protección custodia y difusión del patrimonio documental de euskadi y por supuesto el derecho de la ciudadanía al acceso a los documentos archivísticos y termino

las diputaciones forales y los ayuntamientos están por supuesto implicados en dicha ley es decir una gestión coordinada y eficaz de los archivos desde el máximo respeto a las competencias

se votará primero la del grupo popular votaremos dicha enmienda que como antes he dicho es idéntica al acuerdo que tomó esta cámara

y no esas disquisiciones que usted hace señor reyes

sí gracias presidenta buenas tardes de nuevo a todas y todos en los últimos tiempos hemos venido realizando distintas interpelaciones preguntas dirigidas al lehendakari para que el lehendakari tuviera a bien explicarnos en esta cámara cuál es en concreto

política que defiende para euskadi el modelo de estado que defiende si es que defiende alguno en fin la reforma constitucional que plantea si es que alguna y exigiéndole y pidiéndole que explicara en sede parlamentaria en fin que concrete cómo piensa alcanzar sus objetivos y con quien

respetar la legalidad vigente hemos tratado de intentarlo durante

se posicionara claramente y tuviera la valentía de explicar de una vez y no sé si para siempre a los ciudadanos vascos cuál es

si es que defiende alguno y en qué modelo de estado el partido nacionalista vasco se pudiera sentir a gusto si es que ya digo se podría sentir a gusto en algún tipo de modelo de estado español no

presentara una enmienda de totalidad o de adición o de modificación a esta moción

sobre las distintas propuestas que los distintos grupos proponen en relación a esta cuestión en todo caso nosotros hemos creído indispensable sin esperar a nadie más este debate para que también los ciudadanos conozcan las ideas de unos y de otros y en función de eso también puedan juzgar y puedan en fin

a cuales son las propuestas concretas que plantea cada partido político por lo tanto tiene básicamente dos objetivos por un lado explicar presentar

nuestra propuesta la propuesta de upyd en relación a lo que necesita el país y la reforma constitucional que proponemos y por otro lado y no es menos importante contraponer nuestra propuesta a las propuestas del resto

en abierto y en directo y todo esto evidentemente

de los trabajos que vayamos realizando en la ponencia de autogobierno es una moción que no se plantea contra nadie

queremos decir claramente que en opinión de upyd y dada la situación del país y dada la experiencia acumulada y teniendo en cuenta el devenir de los acontecimientos teniendo en cuenta los

teniendo en cuenta también la evolución autonómica la evolución del estado

teniendo también en cuenta en fin las pulsiones presiones y tensiones nacionalistas existentes y teniendo en cuenta también las desigualdades existentes esta propuesta en nuestra opinión es la mejor posible y es la que necesitan los ciudadanos

nosotros planteamos una reforma de la constitución española para promover un estado federal simétrico y cooperativo conformado por comunidades autónomas todas ellas con las mismas competencias donde estas estén perfectamente claras y delimitadas

las comunidades autónomas y los entes locales y asuma el estado el gobierno de españa

exclusivas e indelegables en materias clave y todo ello con el objetivo de modernizar el modelo de estado acabar con las duplicidades acabar con las ineficiencias actualmente existentes y adecuar ese

a los nuevos tiempos defender la igualdad del conjunto de los ciudadanos y proteger el interés general de todos ellos defendemos por lo tanto

un estado federal un estado federal simétrico cooperativo

confederal ni defendemos un estado federal asimétrico defendemos la corrección del estado actual de las autonomías

en un estado realmente federal y dentro también de una europa federal la reforma constitucional que upyd

del modelo territorial del estado y aunque no están reflejadas en la moción

proponemos algunas otras que ya digo que irían más allá

reforma del modelo territorial del estado una reforma de la ley electoral para poder tener una circunscripción electoral única y listas desbloqueadas

y asegurar la independencia de la justicia es decir que los partidos políticos dejen de parasitar la justicia cosa que ha venido ocurriendo en las últimas décadas

medidas relativas a la transparencia sin ir más lejos que el derecho a la información de los ciudadanos sea considerado un derecho fundamental la supresión de las diputaciones de las diputaciones provinciales y

todo esto es lo que debería recoger en nuestra opinión la reforma constitucional planteamos ya digo todo esto no para contrariar a nadie no para llevar la contraria a nadie no para incomodar a nadie sino para garantizar la viabilidad del estado para garantizar que haya más eficiencia más eficacia más igualdad más transparencia y más defensa general para poder prestar mejores servicios públicos a los ciudadanos y para poder dedicar los recursos públicos a lo verdaderamente importante pensamos que ha llegado la hora de impulsar estas reformas realmente andamos tarde nosotros ya allá por el año dos mil siete planteábamos la necesidad

los partidos políticos proponen reformas para ir hacia una dirección o hacia otra pero a día de hoy creo que nadie prácticamente puede dudar que españa necesita reformar la constitución española las normas están para respetarse mientras están vigentes pero pueden cambiarse y evidentemente pueden cambiarse a través de los procedimientos legales establecidos que es lo que evidentemente nosotros

los problemas se nos acumulan estas reformas en nuestra opinión son imprescindibles son urgentes evidentemente no hace falta decirlo que todo esto necesita amplio político y social evidentemente pero pensamos también que este amplio consenso político y social para alcanzarlo se necesita que cada partido político argumente estas propuestas

ya digo que esta propuesta de upyd no pretende ni contrariar ni incomodar ni llevar la contraria a los nacionalistas tampoco pretende

o acomodarlos o saciarlos tal cosa es imposible sabemos que los nacionalistas tienen sus propuestas algunas de ellas en fin son más o menos respetables pero queremos decir que las nuestras son estas y pensamos que estas son las reformas que el país y la mayoría de los ciudadanos necesita ya digo defender el interés general de los ciudadanos

más igualdad y defender más democracia digamos que todo esto es lo que está recogido en el primer punto de la moción y en el segundo punto de la moción lo que décimos es que

constitución española evidentemente corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles y debe llevarse a cabo a través de los procedimientos legales establecidos respeto absoluto a la legalidad vigente no es una iniciativa contra los nacionalistas no es una iniciativa contra nadie es una iniciativa o una propuesta para mejorar la vida de la gente evidentemente como toda propuesta política

pero perfectamente posible de llevarla a cabo e imprescindible y seguramente urgente en los tiempos que corren

que cada partido político cada grupo parlamentario plantee su propuesta y debatamos sobre todas ellas al fin y al cabo como decía al principio los ciudadanos quieren saber qué es lo que cada partido político propone en todo caso esta es nuestra propuesta queremos debatirla con

gracias presidenta bueno parece claro que lo que debatimos hoy tiene mucho de testimonial

tampoco está de más que de vez en cuando quienes no comulgamos ni con la autodeterminación ni con sus mitos y ritos podamos de vez en cuando explicar nuestras posiciones las propias en la institución que representa al fin y al cabo a todos los vascos y a defenderlas aquí en euskadi desde la legalidad constitucional esa que los ciudadanos vascos respaldamos en las urnas cuando se hizo el referéndum y no desde la subasta de ocurrencias

no vamos a respaldar la moción de upyd sobre su modelo de estado y sobre las reformas necesarias para mejorarlo y no lo vamos a hacer porque no compartimos lo que nos proponen

las hemos madurado en el debate interno como partido las hemos explicitado las hemos dado también a conocer públicamente y pensamos que son lo suficientemente sólidas como para servir de base a un gran diálogo de país en euskadi y en el resto de españa sobre el futuro de nuestro marco político general defendemos como ya he sabido y recoge la enmienda que hemos presentado

que parte de un reconocimiento expreso del valor de la misma de su valor como pacto de convivencia como instrumento para el desarrollo social para la modernización del país

y en euskadi en concreto como motor de arranque de lo que es hoy nuestro marco de autogobierno porque no está de más recordar de vez en cuando que nuestras instituciones estatutarias este parlamento entre ellas son realidades constitucionales y esta constitución nos ha sido útil hasta ahora para avanzar en todos los sentidos

y útil también para los vascos pensamos que es el momento de reformarla profundizando en sus valores en sus potencialidades de progreso

aquel pacto constitucional y proceder a la vez a la reforma de nuestra ley de leyes desde el más amplio consenso político y social y no por un capricho de los socialistas sino porque pensamos que hay necesidad de hacerlo para poder hacer frente a los nuevos desafíos que se nos presentan y que la crisis económica ha puesto especialmente de relieve

y con mayores garantías los intereses públicos para que las inmensas mayorías de este país se vean mejor representadas por un sistema político que necesita con urgencia recuperar la credibilidad perdida una reforma constitucional que responda a las preocupaciones a las demandas y a las aspiraciones de una sociedad que se siente cada vez más alejada de sus instituciones representativas y que salga al encuentro de una ciudadanía que está cada vez más angustiada más empobrecida

una reforma constitucional que permita a las instituciones públicas pertrecharse mejor para defender los intereses de todos

sin tomarse la molestia por supuesto de pasar por las urnas una constitución que recupere su espíritu que dé mayor concreción a sus contenidos sociales sobre todo y a su vocación integradora frente a una derecha económica y política que trata

en letra muerta y necesitamos esa reforma para enfrentarnos desde la política a una realidad que ya no admite paños calientes porque no podemos desconocer que la crisis económica ha creado un enorme malestar social

y no podemos hacer oídos tampoco a un hecho evidente que la sociedad cada vez cree menos en el funcionamiento de las instituciones democráticas y menos también en la capacidad del sistema autonómico para resolver los problemas de fondo de los ciudadanos lo cual ha hecho renacer no solo tensiones sociales muy evidentes

tensiones territoriales y tentaciones paralelas que creíamos haber desterrado con la aprobación de la constitución la tentación centralista por un lado y la secesionista por otra las dos están ahora mismo otra vez en la sociedad española y a todo esto es a lo que hay que dar respuesta

incorporar a la constitución mecanismos que garanticen el estado de bienestar que fortalezcan y amplíen los derechos fundamentales de la ciudadanía los políticos por supuesto y también los sociales que incorpore la protección social y la sanidad pública que garantice los servicios sociales básicos la educación la sanidad las pensiones

cualquiera que sea su origen o lugar de residencia tengan garantizados esos servicios que dé cobertura constitucional

que refuerce la integración política y social de la ciudadanía

teniendo en cuenta el papel protagonista que ha tenido y debe seguir teniendo en el nuevo escenario las comunidades autónomas en la construcción del estado de bienestar y en la consolidación de derechos y servicios públicos esenciales para la gente no es casual

desmantelando poco a poco el estado de bienestar en españa sea el mismo que por la vía de los hechos consumados pretenda también dejar sin contenido la españa de las autonomías

a las comunidades autónomas sus políticas de recortes en algunas materias como educación y sanidad que son de su propia competencia de las comunidades autónomas no podemos permitir que esto siga ocurriendo nosotros creemos

un sistema de éxito para españa hemos sido protagonistas decisivos además en su puesta en marcha

desde las comunidades autónomas cuando hemos gobernado y lo vamos a seguir defendiendo como el único marco político viable de una españa moderna libre democrática y de progreso

es reformar en la constitución la estructura territorial del estado en un sentido federal que entre otras cosas consiga un blindaje de las competencias autonómicas introduciendo mecanismos de cooperación institucional de los que hoy carecemos para evitar en el futuro incertidumbres lagunas improvisaciones o arbitrariedades como la que se están dando en estos momentos para hacer posible lo que ha sido posible de más de treinta años que nacionalidades históricas como euskadi y cataluña

plural pero que comparte muchos elementos comunes eso es lo que los socialistas vascos y los de toda españa defendemos como una contribución para solucionar

no para embarcarnos en querellas nacionalistas inútiles defendemos una reforma constitucional que pueda ser socialmente comprendida por guardar relación directa con la vida diaria de la gente con sus derechos con sus libertades

y con sus posibilidades y esperanzas de progreso algo que tiene que ver muy poco con algunas estrategias de confusión que nos despistan

con la confusión perpetua a la que últimamente somete al país un lehendakari

republicano y por las tardes nos habla de un pacto con la corona porque por lo visto un rey que gobierne

o que asiste con desgana por cierto ampliamente publicitada a la proclamación de un nuevo rey

o que prioriza la exaltación de sentimientos para ocultar la falta de actividad de un gobierno

o que las toma a remolque entre otros del grupo socialista o que deja en manos de los partidos vascos decidir sobre el futuro de nuestro autogobierno que está muy bien

del derecho a decidir y nos dice algo más y es que ese nuevo estatus soberanista que persigue lo sacará adelante pese a quien pese y diga lo que diga madrid según su expresión literal y ese modelo político que nos publicita el lehendakari urkullu y su partido es el que conduce a euskadi

subordinado a la estrategia independentista del presidente de cataluña

se merecen alguna otra cosa se merecen un proyecto colectivo que sea capaz de suscitar nuevas esperanzas el nuestro pensamos que es una aportación
para ese objetivo y por eso lo defendemos en nuestra enmienda eskerrik asko pastor jauna

gracias señora presidenta muy buenas tardes a todos la historia nos demuestra y nos enseña que en tiempos de incertidumbre económica

el populismo el separatismo un nosotros contra ellos en lugar de permanecer abiertas al mundo

pueden empezar a replegarse sobre sí mismas y perder la confianza en el progreso algo de todo esto está ocurriendo en la política vasca por eso nos parece muy oportuno este debate el peligro en el país vasco es que las fuerzas políticas nacionalistas ahonden en esa reacción

además de la convivencia entre vascos el desarrollo la competitividad y la imagen de euskadi el mayor enemigo del aperturismo es el miedo

y algunos están jugando con él para aventurar con ventajismo que nuestro futuro puede y debe ser otro y lo primero que quiero decir es que

ningún planteamiento creo que es en estos momentos de incertidumbre y cambios

y que cada uno dé su opinión y el que quiere la independencia absoluta de euskadi que también lo diga que lo diga abiertamente y que lo plantee abiertamente y que no se ande con rodeos ni eufemismos yo le digo abiertamente nosotros

defendemos un modelo alternativo al nacionalista independentista basado en la visión de una sociedad abierta la vasca que debe recuperar la cohesión y el progreso defendemos que el futuro es mejor afrontarlo unidos en la españa plural constitucional que separados

entre otras cosas porque la historia de españa ha sido y es la historia de un proyecto en gran medida vasco hecho por vascos y que con los vascos será mejor en un mundo interconectado y dependiente y les pido también

tener en consideración lo siguiente los puntos de vista de los vascos son tantos y a menudo tan opuestos unos a otros que nadie puede hablar en nombre de todos ni siquiera de la mayoría

mayorías colectivas a nuestro juicio una de las prioridades de la sociedad vasca de la política vasca es despejar a poder ser con datos objetivos cuál es el mejor modelo de progreso para la sociedad vasca solos o juntos

somos más fuertes permaneciendo abiertos al resto del mundo que estando separados

del siglo veintiuno las ideologías se están transformando de tal manera

reside entre las sociedades abiertas o cerradas entre sociedades donde el protagonismo resida en el individuo o donde ese protagonismo

para dar forma a sus propias vidas porque las sociedades abiertas son un reto de progreso e innovación los flujos de inversión y relación a través de las fronteras siguen creciendo entrelazando los destinos de las naciones más estrechamente reduciendo su protagonismo y cediéndoselo al individuo no podemos obviar esta realidad no la podemos obviar centrando

en construir un país cada vez más cerrado en un mundo cada vez más abierto porque eso es lo que nos está proponiendo el nacionalismo vasco en su conjunto

el marco actual la españa democrática constitucional no solo reconoce y ampara la soberanía de los tres territorios históricos que configuran la euskadi institucional sino que nos dota de un marco competencial inmenso ha llegado el momento de decir las cosas con claridad y con absoluta justicia y objetividad

nos hizo avanzar al conjunto de los vascos desde la nada del estado centralista a una inmensa autonomía similar o incluso superior a la de algunos estados federales europeos y creo que al menos esto debe reconocerse

continuar el esfuerzo que se hizo para su aprobación sometido a referéndum y avalada por una amplia mayoría de vascos el estatuto abre el camino para su desarrollo

y que no puede descartarse por una posición de desdén o de indiferencia eso que tanto les gusta decir de que el estatuto está agotado o que ya no sirve que euskadi necesita un traje nuevo eso que acostumbramos a escuchar es tanto como aquel

prescindir de todo lo logrado para empezar de nuevo un camino sería como abrir ante nosotros un auténtico

pero en cualquier caso lo más honesto señorías es que se expresen que se expresen al conjunto de la sociedad vasca de forma abierta y clara en vez de enredarnos continuamente con el derecho a decidir y a cambio dejándolo en el aire

exigir pedir y pedir en una forma de chantaje para la que francamente no están los tiempos

se había aprobado con los votos del partido nacionalista vasco y bildu que euskal herria tiene derecho a la autodeterminación al día siguiente el lehendakari anunciaba que buscará un acuerdo

la abdicación del rey juan carlos primero el lehendakari decía que se abre un nuevo tiempo para euskadi

y bildu se unían en una cadena humana siguiendo la estela de la consulta catalana en fin observamos

por el lehendakari por la institución que representa a todos los vascos una indefinición de planteamientos que coincide además con un momento de incertidumbre y de profundos cambios sociales políticos y económicos ante este escenario político vasco yo le pido lehendakari

de la comunidad autónoma vasca claridad y definición

del escenario sobre el que la principal institución va a liderar este tiempo que nos toca vivir

en función de cómo nos posicionemos por qué modelo apostemos político y económico o lideramos

hay ciertas claves que sabemos que son garantía de éxito la seguridad la confianza la estabilidad

garantías de progreso y el gobierno vasco es una institución que tiene una enorme responsabilidad

para que todo el mundo sepa a qué atenerse y no mantener sospechas que nos acaben explotando en resultados electorales en un escenario político como el vasco

en torno al debate soberanista que un día sí y otro no

aprovechando la crisis creemos que es urgente clarificar y definir el futuro de euskadi

y caminar juntos porque nos estamos jugando señorías

el partido nacionalista puede jugarse muy legítimamente su estrategia partidista pero no puede jugar con el futuro del conjunto de los vascos y es necesario definir las cartas es un momento de política de estado y no de política de partido

y no de intereses partidistas porque estamos viviendo un momento crucial para el futuro de la sociedad vasca

para salir de esta noria en la que vive instalada la clase política vasca sobre cuál es nuestra identidad y nuestros sentimientos deben definirse lehendakari

pero sí al partido gobernante al que tiene la responsabilidad de liderar en este momento la sociedad vasca euskadi debería renovar su proyecto de futuro sellando de una vez su modelo alejándose del victimismo como en el que está instalado en los últimos días el lehendakari y encarando un futuro

de acuerdo a la realidad de un mundo que es el que es

de la única y caduca idea que esgrime el partido nacionalista gobernante que plantea a los vascos un país vasco en miniatura un país en permanente conflicto

un país al que dirigen con menos territorio

menos recursos menos interacción menos estímulos menos que compartir menos personas con las que identificarse y en definitiva un mundo más pequeño voy terminando señora presidenta los vascos tenemos la oportunidad de conducir nuestro futuro

que nos rodea y por eso creo que tenemos poco tiempo

de esa gran parte de la sociedad vasca que sabemos que es mayoritaria que quiere enfocar su vida compartiendo y renovándonos que quiere estabilidad y garantías

confiar en liderazgos e ideas nuevas que nos saquen de aquí y mi obligación lehendakari

de esos períodos de nuestras vidas de la política de nuestras instituciones

muy importantes y todavía lehendakari no hemos escuchado cuál es la posición
del partido nacionalista vasco muchas gracias eskerrik asko quiroga andrea